de conformidad con lo establecido en el artículo dos apartado dos de la ley tres barra mil novecientos ochenta y cinco de veintisiete de febrero por la que se crea y regula la institución del ararteko ha designado ararteko a don manuel lezertua

prometo cumplir con lealtad y de acuerdo con las leyes las obligaciones del cargo que asumo al servicio de euskadi

gracias presidenta lehendakari señorías por fin

la ley de vivienda ha sido un recorrido largo

aprobando esta ley ley que en su momento impulsamos los socialistas hace ya

y por eso el tiempo transcurrido no hubiera sido posible entonces su tramitación

por lo tanto desde el primer momento se ha revelado como imprescindible la aportación y la colaboración de ambos grupos para el alumbramiento de esta ley por lo tanto desde aquí quiero expresar mi reconocimiento y mi agradecimiento a ambos grupos por sus aportaciones y por favorecer el alumbramiento como digo de esta ley

esta prolongación en el tiempo ha estado presidida por una atmósfera dilatoria que ha tratado de impedir de un modo u otro que esta ley llegara

en este recorrido se ha podido ver con nitidez la fobia que tiene el pensamiento liberal a la concreción de los derechos para las derechas

el momento de su concreción el momento de garantizarlo ahí aparecen los problemas y este es el caso la ley de vivienda que pretendemos aprobar hoy empieza por declarar el derecho subjetivo a la vivienda no hay mayor concreción sobre el derecho subjetivo se puede hablar tanto como se quiera pero la ley que aquí vamos a aprobar zanja cualquier

y plantea claramente la aplicación del derecho subjetivo y esta declaración de derecho subjetivo es la que pone en concreto el gobierno vasco que ha mostrado en todo momento su discrepancia

plantea nada menos que un efecto llamada mundial naturalmente que para decir esas cosas para decir esas cosas quiere decir que existe un grado de paroxismo

porque la ley no trata de ser una amenaza para nadie trata de guiar políticas públicas que hagan posible el derecho a la vivienda y para ello define su función social y seguidamente expresa que la provisión de vivienda y de los alojamientos destinados

como un servicio de interés general y este título habilitante es el que da lugar a las intervenciones que están previstas intervenciones

y de ahí los recursos de inconstitucionalidad con los que amenaza esta es la gran cuestión la propiedad el gobierno español a través de un informe del ministerio de fomento que envió en octubre del dos mil trece alertaba ya de la eventual inconstitucionalidad de la proposición de ley de vivienda

definen contenidos esenciales de la propiedad y reclama para el estado esa competencia

no hay la más mínima referencia al artículo cuarenta y siete principio rector que habla del derecho a la vivienda ni siquiera del artículo treinta y tres que habla de la función social de la propiedad de nuevo la vieja distinción entre privilegiados y excluidos que ha marcado durante siglos el escenario social de la historia

que existen medios para eliminar el hambre y la miseria en el mundo y que si eso no ocurre es por la organización socio política de la tierra la creencia y la voluntad de que es posible transformar la sociedad

el artículo cuarenta y siete no solo proclama el derecho a la vivienda sino que impone a los poderes públicos la obligación de establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho

y es que el propósito de esta ley no es otro que dar cumplimiento a dicho mandato constitucional mientras que el propósito de la derecha es que el derecho a la vivienda no pase de ser de una

los instrumentos con los que se pretende favorecer la realización concreción y garantía de dicho derecho son objeto de los peores calificativos por ejemplo

es la cuestión de la vivienda vacía y la imposición de un canon a las propiedades de viviendas así declaradas el fenómeno de las viviendas vacías por sí mismo daría para un largo debate pero a lo que la ley hace referencia mencionaré un elemento

teniendo en cuenta que para el pensamiento liberal el derecho de propiedad es un señorío absoluto que no puede ser conturbado por nadie ni siquiera por los poderes públicos pero aquí se olvida

reza el artículo siete del código civil y esto es lo que pretende la ley precisamente no amparar el abuso del derecho y el ejercicio antisocial del mismo que supone que constituye que tener viviendas vacías a lo largo del tiempo habiendo necesidad de las mismas

que existe un desajuste entre la necesidad de vivienda y el parque existente y la decisión de actuar sobre los desajustes del mercado exige considerar tanto desde la perspectiva de la oferta como de la demanda si bien es verdad que es un problema identificar con exactitud el número de viviendas vacías porque primero es un concepto que hay que delimitar

y según el observatorio vasco de vivienda teníamos en dos mil trece un ocho coma siete por ciento de vivienda existente en situación desocupada

y esto tiene su importancia en el debate sobre la propiedad porque si bien una vivienda es una propiedad privada no es menos cierto

que no son propiedad privada sino bienes públicos y colectivos y por lo tanto dos bienes jurídicos a armonizar

esta obligada necesidad de conjugar intereses no debe hacer obligar el principio rector de la política social del artículo cuarenta y siete de la constitución española

por una parte un número importante de viviendas vacías solo puede ser entendido como un fenómeno cargado de connotaciones negativas

al menos aparente solo puede tener como finalidad probable esperar unas plusvalías de otra parte no estaría la propiedad de la vivienda vacía incumpliendo solo con la función social sino que además la amenaza porque el comportamiento especulativo conduce inexorablemente a la alteración del precio de las cosas en este caso de las casas para la concepción de la ley hay que entender que la consideración de vivienda es una porción de espacio urbano de uso privado destinado a ser usada como alojamiento de un hogar

que la definición de vivienda vacía es un concepto jurídico indeterminado incluso diríamos difuso es verdad porque cabe en muchas situaciones que expliquen tal situación sin embargo es posible llevar a cabo una concreción ya lo pretendía el artículo ochenta y nueve punto dos del anteproyecto de ley de garantía del derecho ciudadano a una vivienda digna

en gobierno del señor ibarretxe por lo tanto cuando planteaba desarrollo

de en qué situaciones se podía definir una situación de vivienda vacía ya daba una

lo que hace es remitir a desarrollo reglamentario en esta cuestión respecto de la imposición del canon como del alquiler forzoso en estos casos no son distintas estas medidas por

de las que se adoptan en otras partes en europa señaladamente un recorrido por la diferente legislación nos daría como resultado que la ley que aquí se presenta está en línea con la legislación más eficaz en orden a garantizar el derecho a la vivienda

y por tanto digamos que estas figuras jurídicas se asientan en una cultura política homologable hay otros aspectos relevantes a destacar sí como es la política del alquiler como forma de entender las políticas públicas de vivienda y eso adquiere concreción sobre este particular también podría extenderme pero basta decir que la ley apuesta por esta fórmula como única alternativa de política de vivienda con un periodo de adaptación de cinco años

y otras intervenciones como la creación de un organismo autónomo en el que confluyan todas las sociedades públicas e integrar los diferentes programas y políticas de vivienda

medidas legales para intentar hacer efectivo el derecho a la vivienda según recogen numerosos instrumentos de derecho

en materia de derechos humanos tenemos la declaración universal de derechos humanos de mil novecientos cuarenta y ocho en el artículo veinticinco pacto internacional de derechos económicos y sociales de mil novecientos sesenta y seis convenio europeo de derechos humanos carta social europea de mil novecientos sesenta y uno y

su política de vivienda no ha sido capaz de dar adecuado cumplimiento al mandato constitucional y a los compromisos internacionales adquiridos en la materia

que el sistema de provisión de viviendas reúne las características de un estado social débil en el que el mercado es quien asigna y regula de manera principal esta necesidad básica para las personas esta política hunde sus raíces en el régimen franquista y no se ha modificado sustancialmente desde entonces

ya desde los años cincuenta muchos países europeos experimentaron una fuerte intervención del poder público sobre el mercado con el objeto de dar respuesta a las necesidades sociales

una auténtica política social en materia de vivienda la ley que aquí se presenta trata de superar este déficit democrático y social

porque en materia de vivienda solo por ley autonómica se puede legislar el estado persiste en su voluntad de negar esta capacidad a las autonomías invocando el ciento cuarenta y nueve punto uno punto trece que habla

obsesiva a todo lo que es concreción de los derechos lo que hemos conocido

por el contrario una política pública basada en una perspectiva de derechos habitacionales obliga a reconocer a la vivienda

tanto para los poderes del mercado como para los poderes del estado

de la ley que este dictamen aún incompleto por las dificultades de negociación y la complejidad del propio texto pretende por lo tanto quiero agradecer en este momento

y recordar que este es el fruto colectivo en el que han participado muchas personas

que han contribuido a generar una conciencia sobre este estado de cosas y por lo tanto a todas esas vanguardias ciudadanas que han logrado mantener en alto la reivindicación de un derecho efectivo a la vivienda y a todos los que han colaborado de alguna manera o de otra haciendo sus aportaciones a este texto que vamos a alumbrar

por todo ello nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna taldeen txanda

señor lehendakari señores consejeros hace dos años decidimos votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley traída a esta cámara por el grupo socialista la razón fundamental tal como explicábamos entonces euskadi no tiene una ley de vivienda y que euskadi necesita una ley de vivienda y aquel texto que nos traía el grupo socialista podía ser la base de una futura buena ley de vivienda en el debate que produjo en la comisión de vivienda

popular recordaba acertadamente que euskadi no tiene aún una ley de vivienda porque ni el partido nacionalista vasco ni el partido socialista de euskadi habían sido capaces durante años de alcanzar los consensos mínimos para lograr ese objetivo compartido escuchándola

que ella explicaba cierto me dije a mí mismo que upyd había hecho bien en tratar de hacer todo lo posible para que la historia no volviera a repetirse y me dije a mí mismo que la actitud adoptada por upyd desde la toma en consideración de este proyecto de ley hasta el debate de hoy había sido la correcta

constructiva dialogante y en positivo y el objetivo a alcanzar evidente aprobar la mejor ley de vivienda posible la política

asumir responsabilidades y dar la cara y es lo que upyd ha hecho en todo este proceso cuyo colofón se produce hoy pronto percibimos que había

que no hubiera ley de vivienda que se aprobara una ley conservadora y poco ambiciosa que no supusiera ningún avance relevante y tercera opción tercera posibilidad

valiente y justa y que tuviera como objetivo resolver los problemas de los ciudadanos vascos en materia de vivienda nosotros hemos hecho todo lo posible para tener una ley de vivienda

pero creo que al menos por nuestra parte hemos hecho todo lo posible para que el texto pudiera finalmente recoger tres asuntos que nosotros consideramos absolutamente esenciales

el derecho subjetivo a una vivienda digna dos que toda la vivienda pública sea en alquiler tres medidas para luchar contra los desahucios que han padecido miles de ciudadanos durante los últimos años en ese sentido nuestro voto ha sido decisivo para lograr objetivos esta ley introduce otras cuestiones que nos convencen menos o que nos suscitan dudas o que nos parecen menos importantes pero la introducción del derecho subjetivo a una vivienda digna que todos los recursos en materia de vivienda sean dedicados al alquiler y medidas que puedan

lo compensan todo para el logro de estos objetivos se han basado las negociaciones mantenidas con el grupo socialista a quien agradezco su talante en la persona del señor

por tanto siendo el texto inicial un texto muy a tener en cuenta desde upyd planteamos una batería de enmiendas parciales que incidían en diversas cuestiones la supresión de la figura de los alojamientos dotacionales la apuesta por la vivienda pública

se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad atención especial aquellos colectivos que se encuentren en peor situación económica o en riesgo de exclusión social la defensa del derecho subjetivo sin duda uno de los grandes avances que establece la ley

tienen necesidad de vivienda aquellos que siendo titulares de su vivienda habitual se encuentren en curso en un procedimiento de desahucio

sin incurrir en riesgo de exclusión social y además aquellos arrendatarios

a los pagos del arrendamiento sin incurrir en riesgo de exclusión social

en los supuestos de necesidad de vivienda de personas en especial circunstancia de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria de vivienda

previa del prestamo con el objetivo de recuperar el dinero público empleado en la promoción de la vivienda protegida y garantizar así el derecho a la vivienda del inquilino apoyo a la creación de un único registro de viviendas de protección pública

autónoma supresión de la propuesta socialista para la creación del fondo de garantía y compensación la supresión de las sociedades urbanísticas de rehabilitación la supresión del depósito de fianzas propuesto por el grupo socialista el apoyo a la creación

deshabitadas el apoyo al alquiler forzoso de la vivienda deshabitada obviamente en determinadas circunstancias y bajo el riguroso cumplimiento de determinados requisitos inicialmente la supresión de la propuesta socialista cierto para la expropiación forzosa del uso temporal de viviendas incursas en procedimientos de desahucio

aunque finalmente hemos llegado a un texto alternativo que mejora y completa la redacción inicial y que garantiza su seguridad jurídica es lo que tiene la política que hay que negociar y llegar acuerdos y en ocasiones el rival político

de la viabilidad y de la necesidad de sus propuestas si echamos la vista atrás podemos comprobar la coherencia de upyd ya que gran parte de las ideas recogidas en esta ley de vivienda han sido defendidas de un modo o de otro

a través de la presentación de determinadas iniciativas proposiciones no de ley mociones y también propuestas de resolución en los diferentes debates monográficos que se han celebrado en los últimos años en esta cámara

de dos mil once con motivo de la celebración de un debate monográfico sobre vivienda nosotros proponíamos y defendíamos la siguiente resolución

el derecho de la ciudadanía a disfrutar de una vivienda digna y adecuada el principio en auténtico derecho subjetivo exigible ante los tribunales para aquellas personas con mayores dificultades de acceso lo defendíamos ya por lo tanto

y decíamos que respecto a la disyuntiva entre vivienda protegida en alquiler versus vivienda protegida en régimen de propiedad seguimos defendiendo la primera opción

de duda se nos dice desde el gobierno vasco esto lo decía yo en abril de dos mil once gobierno socialista que en el caso de la vivienda protegida en régimen de alquiler

a las instituciones públicas a afrontar este tipo de acciones pero pensamos decía yo

evidencia una visión mercantilista de la política de vivienda que nosotros rechazamos y decíamos que en upyd tenemos claro que la política de vivienda que se acerca más a la justicia social es la que se basa en poner al servicio de los ciudadanos con menos ingresos y de los jóvenes que buscan su emancipación

para ser utilizado durante unos años y por los que paguen unas rentas proporcionales a sus ingresos y su situación familiar y seguíamos diciendo

upyd aboga por una política de vivienda pública exclusivamente en alquiler

recursos de modo que sean las personas más desfavorecidas las que tengan en cada momento derecho a una vivienda es más decíamos el gobierno vasco ha anunciado que permitirá que la administración imponga un canon y el alquiler forzoso de la vivienda deshabitada los ayuntamientos podrán imponer un canon sobre las viviendas deshabitadas además

en ámbitos de acreditada demanda y necesidad de vivienda y yo decía lo compartimos eso sí añadíamos que el gobierno vasco debe explicar cómo pretende superar determinadas dificultades así cómo demostramos que una vivienda está realmente deshabitada

de dos años cómo controlamos los posibles contratos fraudulentos que puedan registrarse en el gobierno vasco para evitar el canon entre otras estas son cuestiones que

clarificarse si bien muchas de las enmiendas parciales presentadas por upyd no han sido aceptadas no han sido incorporadas al texto

damos por satisfechos con lo finalmente incluido en la ley y con las enmiendas de transacción firmadas en su momento con el grupo socialista todo ello posibilitará

a la ley de vivienda en concreto firmamos las enmiendas de transacción con el grupo socialista para la creación de un único organismo autónomo que integre las diferentes empresas públicas y organismos actualmente existentes en materia de vivienda

de alquiler recogiendo un espacio temporal de cinco años para que toda la vivienda pública sea exclusivamente de alquiler ya digo que ya

en el año dos mil nueve yo mismo presenté una proposición no de ley instando al gobierno vasco a que hiciera posible que toda la vivienda pública

en aquel debate del año dos mil nueve recuerdo perfectamente quedé absolutamente solo en la defensa de esos planteamientos seis años después podemos decir

ese objetivo seis años después hemos logrado el objetivo de que toda la vivienda pública sea destinada al alquiler o que vaya a ser destinada en un futuro muy cercano al alquiler además gracias a esas enmiendas de transacción se considerará que tienen necesidad de vivienda aquellos que siendo titulares de su vivienda habitual esta se encuentre en curso en un procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria

sin incurrir en riesgo de exclusión social además

circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio por ejecución

se podrá aplicar el procedimiento de expropiación temporal del uso de la vivienda

en los artículos setenta y tres y setenta y cuatro sin ser exigible los requisitos señalados en el apartado tres

del arrendamiento en el artículo setenta y tres punto uno que regula la expropiación forzosa del uso temporal de viviendas incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria sin duda una medida valiente una medida progresista que puede servir de presión para que la entidad financiera

y que cumple todas las garantías constitucionales esta ley cumple sin lugar a dudas todas las garantías constitucionales porque nos hemos encargado de que

que finalmente se ha incluido en la ley siendo nuestro voto decisivo para la aprobación de esta ley no podíamos dar la espalda

gracias a nuestro voto y a pesar de que no han sido aprobadas como decía antes muchas de nuestras enmiendas parciales y de que no compartimos el cien por ciento de la ley pensamos que la sociedad vasca va a disponer

para hacer frente a sus necesidades de vivienda y para luchar

de los desahucios y esto es extraordinariamente importante para upyd y para un servidor si esta ley va a impedir que se produzcan

conjuntamente sería un éxito extraordinario haber mirado para otro lado habría sido sinceramente imperdonable

para otro lado bastante ha sufrido bastante ha sufrido demasiada gente en euskadi consecuencia de los desahucios

un servidor hubiera mirado para otro lado y no se hubiera terminado mojando para aprobar esta ley que incluye medidas contundentes de lucha contra

firmadas con el grupo socialista somos por lo tanto coherentes con nuestra trayectoria

la habilitación de un buen texto legal por tanto con nuestro voto decisivo vamos a posibilitar tres cosas fundamentalmente uno la implantación del derecho subjetivo a disfrutar de una vivienda digna

derecho recogido en la propia constitución española que deben desarrollar las comunidades autónomas derecho que ya planteó el partido nacionalista vasco en su momento

y algo que está recogido en su propio programa el gobierno vasco deberá decidir vía reglamento cómo se plasma y se hace realidad ese derecho dos que toda la vivienda pública sea en alquiler una reclamación histórica de upyd defendida por primera vez en dos mil nueve en aquel debate

como decía antes y los plazos de amortización son tan largos que complican a las instituciones a afrontar

a lo que respondí literalmente que esa argumentación evidencia una visión mercantilista de la política de vivienda que nosotros rechazamos

en materia de vivienda se destinarán al alquiler se nos dice por parte del partido nacionalista vasco y por parte del gobierno que esto supondrá dedicar mucho dinero público muchos recursos a la vivienda efectivamente y así tendrá que ser de la misma forma que no se cuestiona que debe destinarse mucho dinero público muchos recursos públicos a la sanidad o a la educación o al gasto social también deberán dedicarse recursos públicos

este derecho que nosotros consideramos absolutamente fundamental y que está recogido en la propia constitución española y tres poner en marcha mecanismos jurídicamente seguros y políticamente muy avanzados para luchar

creo que de esta forma cumplimos el programa político de upyd he tenido algunas dudas

proceso ha sido una ley polémica discutida

y por parte del partido nacionalista vasco se han dicho muchas cosas se ha criticado contundentemente esta ley y el propósito que en ella se concreta creo que han sido declaraciones injustas creo que hemos tratado de hacer la mejor ley posible y yo he cumplido la máxima que tengo desde que estoy en el parlamento siempre
el programa político de upyd y en caso de duda estar siempre cerca de los más humildes gracias eskerrik asko maneiro jauna

gracias señora presidenta egun on guztioi bien tomo la palabra para exponer la posición de mi grupo tanto

a las enmiendas para defender las enmiendas que este grupo ha presentado a la misma

hacerlo dejando claro un extremo desde el principio desde el principio desde el grupo popular queremos manifestar que siempre hemos dicho

era necesario y es necesario que euskadi cuente con una ley de vivienda lo hemos defendido en esta cámara en muchísimas ocasiones una ley que articule los mecanismos

el derecho a contar con una vivienda digna y adecuada derecho como se ha dicho aquí constitucionalmente reconocido en el artículo cuarenta y siete derecho además que con arreglo

nuestra comunidad autónoma está claro y también se ha dicho aquí que existe una demanda no satisfecha y que corresponde a los poderes públicos satisfacer esa demanda y muchos han sido los intentos de los distintos gobiernos por aprobar una ley de vivienda intentos que siempre han sido in extremis

de un vía crucis de innumerables estaciones

a finales de junio de dos mil doce pero su debate no pudo tener lugar porque finalmente en agosto se convocaron las elecciones y como no se pudo aprobar aquel proyecto de ley se presentó como proposición de ley porque la proposición que se presenta

que no se hizo ningún trabajo previo de negociación y que cuando

no contó con muestras de adhesión por parte de esta cámara sino más bien

pero en ese momento el propio consejero ya dijo que no le interesaba que probablemente no gustaría ni al partido nacionalista vasco ni al partido popular pero no se preocupó

pensamos que pretendía que esa ley naciera muerta pretendía ya desde ese momento

pero cuando el arco parlamentario ha cambiado y el partido socialista estima que puede contar con

con los que parecen ser sus socios naturales trajo a esta cámara el anterior proyecto en forma de proposición no de ley y tampoco ahora se ha buscado el consenso no por mucho que aquí se diga tampoco ahora se ha aceptado ni se ha buscado el consenso se han admitido por parte

tan es así que muchas de las sesiones de la ponencia parecía que el proponente de la iniciativa era bildu y no el partido socialista y se ha buscado

de quien podía hacer que la suma diese el voto de upyd y así vemos como esta ley no es fruto del consenso como decía es simplemente el resultado de una suma aritmética de los parlamentarios de bildu

la política se ve reducida a esto a sumas aritméticas a que den los números sin importar qué hay debajo de esos números sin importar el resultado que se pueda obtener porque que desde el grupo popular reconozcamos que es necesario una ley de vivienda ello no quiere decir que valga cualquier ley de vivienda no y desde luego esta a nuestro juicio

lo dije cuando se tomó en consideración esta ley por múltiples razones en primer lugar por razones de técnica legislativa un instrumento de esta envergadura

como es la vivienda debería de haber contado con la tramitación

de un proyecto de ley que hubiera hecho que fuera con los informes que acompañan a las leyes pero no

y ello como digo hubiera permitido contar con informes respectivos con bases fácticas y no con esa remisión genérica que se hace en la exposición de motivos de tenemos en cuenta los estudios y análisis de demanda realizados en el momento de la redacción del presente texto legal

en esos informes que se tiene pero como decía se presenta esa proposición que en su día fue un proyecto de ley a pesar

en los informes que emitieron muchos organismos informes preceptivos tenía muchos reparos pero no se presenta se presenta una proposición que es mimética

con una única novedad una única novedad que es la del decreto

pero nosotros seguimos dudando de la constitucionalidad de lo que hoy aquí se va a aprobar

esta proposición la política de vivienda llevada a cabo por los distintos gobiernos que ha contado euskadi ha sido un rotundo fracaso porque no es suficiente con tener competencias

aquí nunca se ha hecho la gestión de la política de vivienda desde luego ha sido todo menos eficaz ha sido un rotundo fracaso pero es que la política que va a salir después también está abocada al fracaso porque parte de falsedades parte de que la solución al problema de la vivienda radica

derecho subjetivo que luego no es tal porque luego en la propia ley se establece que no todo el mundo se tiene que hacer por tandas se tiene que hacer por fases pero en fin

como digo creemos que va a traer consigo además de un nuevo fracaso mucha frustración en la ciudadanía por las expectativas generadas que no van a poder ser satisfechas

como se ha dicho aquí y es verdad que se obliga a los poderes públicos a que se satisfaga ese derecho pero de verdad para que los poderes públicos

tenemos que declarar todos los derechos subjetivos todos los derechos reconocidos en la constitución como derechos subjetivos que puedan ser reclamados ante los tribunales y que si no pueden ser reclamados ante los tribunales eso

no van a hacer nada por satisfacerlos de nada además sirve declarar el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo si luego no se le da satisfacción porque como digo las declaraciones en un papel quedan muy bien pero lo importante para los ciudadanos es la satisfacción

y la cuestión como digo no está en la exigencia sino en ponderar los cuantiosos medios económicos y la posibilidad social de disponer de los mismos en la presente situación económica porque de no hacerlo así supone un ejercicio de legislación voluntarista y alejada de la realidad es por tanto como digo necesario tener en cuenta las posibilidades económicas y presupuestarias de las instituciones implicadas no solo del gobierno vasco

que la configuración del derecho de vivienda como un derecho subjetivo traerá consecuencias para el gobierno vasco primera línea en las demandas de los particulares pero también para los municipios que ocuparán la segunda línea en la demanda de los mismos y con qué recursos

porque como decía la propia ley reconoce que la satisfacción de este derecho se hará de forma

por tramos pero se tiene que materializar y el papel como digo lo aguanta todo

que populismo y demagogia es necesario contar con recursos presupuestarios es necesario contar con recursos humanos y organizativos máxime

si no es posible sea suplida por una prestación económica que según se nos informó puede suponer más de setecientos millónes hasta el dos mil veinticinco

es necesario saberlo si para ello si para contar con esos recursos nos vamos a tener que endeudar más si vamos a tener que subir los impuestos o si vamos a recortar de otras partidas del gobierno vasco y de cuáles

y esta ley contempla además una única fórmula que es el alquiler con el que este grupo no está de acuerdo es verdad que la demanda se está invirtiendo

no todos y nosotros aunque compartimos que debe priorizarse la fórmula del alquiler tampoco a nuestro juicio debe ser la única fórmula

en un primer momento por qué era prioritario el alquiler y ahora ya por qué solamente va a ser

además esta ley pretende sustituir la acción de los poderes públicos o mejor dicho la inacción que los distintos gobiernos tanto los nacionalistas como el gobierno socialista han dejado patente y trasladar la carga al ámbito privado porque existían viviendas de protección pública desocupadas

y sin embargo se penaliza a quienes las tienen vacías pero desde luego no se ha puesto todas esas viviendas vacías a disposición

además esta ley tiene grandes dosis de inseguridad jurídica hay invasiones competenciales con el estado

hay disposiciones contrarias a la autonomía municipal creemos que se exceden las competencias legislativas del parlamento vasco en varias materias en el estatuto de la propiedad en las expropiaciones en facultades tributarias y en el régimen jurídico de las administraciones públicas la comunidad

en materia de vivienda por cuanto esta puede afectar a la propiedad y regular el estatuto jurídico del derecho de la propiedad es competencia del estado como de manera reiterada

y dieciocho como digo corresponde al estado por lo tanto los artículos relativos al alquiler forzoso y otros reguladores de instrumentos públicos de intervención

inciden de manera directa en ese estatuto de la propiedad que como digo no le corresponde regular a esta cámara lo mismo sucede con el canon de vivienda deshabitada el alquiler forzoso y las expropiaciones forzosas que chocan como digo con ese derecho

y en lo relativo a la expropiación de viviendas afectadas por deudas hipotecarias como he dicho antes claramente el tribunal constitucional se ha pronunciado al respecto y como digo también influye en la autonomía municipal por lo tanto como digo esta ley

de inseguridad jurídica es una ley que descansa en la penalización en el castigo y desde este grupo siempre hemos dicho que somos mucho más partidarios de medidas de fomento que de medidas de castigo

hemos propuesto ciento setenta y ocho enmiendas de las cuales han sido aceptadas una cuarentena y tres han sido transadas todas ellas en el sentido de plasmar

contenían aspectos de mejor definición de inclusiones a nuestro juicio necesarias o de redacciones más adecuadas existe otro grupo de enmiendas dirigidas a garantizar ese adecuada reparto competencial y autonomía municipal a garantizar en definitiva la seguridad jurídica otras son fruto de propuestas que en su día

organismos como por ejemplo la oficina de control económico otras que no solamente las presentamos nosotros sino también coincidieron y finalmente han desaparecido para acabar

otras iban dirigidas a que la función social de la vivienda se configurase de modo coherente con las prescripciones constitucionales del derecho a la propiedad con relación a garantizar el derecho a la vivienda que nosotros sí creemos porque lo hemos dicho antes que los poderes públicos deben garantizar ese derecho a la vivienda hemos propuesto el reconocimiento del derecho al disfrute a una vivienda digna adecuada y accesible a todos aquellos que tengan vecindad administrativa con una antigüedad de tres años en euskadi

las satisfacción de ese derecho a los poderes públicos de nuestra comunidad pero como digo sin reconocerlo como un derecho subjetivo porque como he dicho antes hacerlo sin ponderar

constituye un ejercicio de voluntarismo político alejado de la realidad

jóvenes mujeres víctimas de violencia de género personas con movilidad reducida o víctimas del terrorismo que quieran volver a euskadi

que no se excluyan como he dicho antes otras fórmulas distintas del alquiler para satisfacer la necesidad de vivienda hemos puesto como digo de manifiesto

reducir la misma no estamos tampoco de acuerdo más allá de su seguridad o no con la imposición del canon o el alquiler forzoso porque

medidas que esas sí garanticen más allá de penalizar la apuesta en el mercado de viviendas desocupadas además

en otras ocasiones el castigo no debe de ser el objetivo de las administraciones públicas no lo debe ser lo que debe de ser es la satisfacción de los derechos y creemos como digo

en el mercado es mucho más efectivo que simplemente imponerles un canon hemos procurado que en lo relativo a la rehabilitación de vivienda

y no afectar al final al derecho de la propiedad hemos

renta estandarizada es decir que se tenga en cuenta el número de miembros de la unidad familiar o convivencial hemos propuesto enmiendas también

a evitar ese excesivo intervencionismo de la administración así como a garantizar la utilidad social de las viviendas de protección pública

a algo que siempre ha salido cuando se ha debatido de vivienda en esta cámara y algo que yo creo que es una necesidad y es que

y es necesario una modificación de la ley del suelo porque la actual es absolutamente ineficaz

conjuntamente deben abordarse para garantizar el derecho a la vivienda de todos los vascos de los que tienen menos recursos económicos y de que aquellos

con excesivos recursos económicos sin embargo no pueden acogerse a viviendas de protección pública pero que tienen derecho a poder acceder a una vivienda a un precio adecuado y la actual ley del suelo no lo garantiza no lo garantiza esta ley

las diferentes realidades de cada uno como digo no ha servido para ese objetivo esencial por ello nosotros hemos propuesto

por cierto ley del suelo que se trajo aquí su intento de reforma también en la anterior legislatura por parte del grupo socialista pero de esa ya se ha olvidado totalmente y además se dijo

se ha olvidado totalmente y esa ley del suelo de momento no ve

que se aminoren las cargas urbanísticas a los ayuntamientos precisamente para facilitar la construcción

y que estas tengan un precio adecuado y también que esas concesiones sean fijadas por el ayuntamiento teniendo en cuenta las características de su término municipal

precisamente para que los porcentajes destinados a vivienda de protección sean disminuidos porque el excesivo porcentaje como digo igual que esta ley de vivienda

pero luego los resultados han sido los que han sido que las viviendas durante mucho tiempo su precio ha estado absolutamente disparado o si no simplemente momentos

se construyen por lo tanto como digo es necesario reducir esas reservas de suelo destinadas a viviendas de protección públicas con el fin de incentivar

de viviendas libres pero que tengan precios asequibles a la ciudadanía porque lo que no podemos es proteger a uno y dejar absolutamente desprotegidos a otros

la verdad es que muchos han sido los debates que se han producido en esta ley de vivienda la casa se empezó por el tejado debería haber sido un proyecto debería de ir acompañado de una serie de informes debería de haber acompañado de unas comparecencias y luego después ver

yo quiero agradecer a todos aquellos que han comparecido en la comisión para hacer sus aportaciones todas ellas han sido

y termino como empecé diciendo que nosotros desde el grupo popular hemos creído necesario que haya una ley de vivienda pero una ley efectiva una ley que contenga instrumentos no medidas voluntaristas que sobre el papel

muy bien pero que luego no solamente puede que se queden solo en el papel
sino que al final sean únicamente papel mojado nada más muchas gracias eskerrik asko llanos anderea

naturalmente nuestra posición política no puede diferir mucho de lo que se ha expuesto en el dictamen y se decía en él cuáles han sido las fuerzas

espíritu que anima la ley que vamos a aprobar esas fuerzas se han expresado

por lo tanto no me voy a extender sobre ello quiere decirse que se afirma la necesidad de una ley en estos tiempos

todos esos episodios donde el desalojo y el lanzamiento forzoso de muchas personas de sus casas lo hemos podido monitorizar

pero para la derecha para el partido popular los derechos como decía en la explicación del dictamen son esos meras invocaciones

señora llanos hay gran parte de la doctrina que entiende que está in sito en el propio artículo cuarenta y siete de la constitución qué es lo que ocurre que su justiciabilidad su exigencia solo se puede hacer con el arreglo de las leyes y qué casualidad

solo pueden legislar las autonomías pero es que cuando se llega a esta situación entonces se dice no hágase una ley en la que se favorezca el derecho pero no se concrete

el papel lo aguanta todo el papel en el que van impresas las leyes no son papeles corrientes y molientes

instrumentos que obligan a los poderes públicos y a la ciudadanía por lo tanto no es un papel cualquiera

leyes decía la señora llanos que hombre esto se tenía que haber tramitado pero claro es que los socialistas esperamos a que el gobierno en su momento a la hora de plantear el calendario legislativo hablara de ello no lo hizo y en dos ocasiones por cierto el partido nacionalista vasco que gobierna tuvo ocasión anterior también un proyecto de ley de características parecidas no lo sacó en la oposición no lo planteó cuando regresó al gobierno

y propusimos una ley de vivienda claro que es verdad que el trámite cuando es proposición no es el mismo que es el proyecto pero de eso no nos podrá culpar a nosotros

habla de los recursos efectivamente los recursos por definición siempre son escasos y limitados pero se trata de que a la hora de asignar los mismos hay que establecer una jerarquía

y no sé si usted lo convendrá o no con nosotros pero el derecho a la vivienda para nosotros es un derecho básico

excluidos es verdad que el partido socialista inicialmente solo hablaba que en materia de política de vivienda el alquiler fuera preferente

su representación para hacer efectivamente volcar hacia la tendencia a que sea una política de alquiler pero esto tampoco es una ocurrencia fruto de los acuerdos de última hora

suficientemente acreditadas y homologadas en europa y dan respuesta a los problemas habitacionales y a las necesidades de vivienda de manera bastante eficaz por lo tanto no se trata como decía en la exposición del dictamen de una ocurrencia o de una genialidad está asentada en una cultura política bien homologable la cultura del alquiler

como decía ha llegado el dictamen no completo con la idea de la ley porque las negociaciones la propia complejidad y las dificultades ha dejado algunas cosas digamos pendientes de aprobación en este pleno

claro mientras que el registro de contratos no daba lugar a ninguna controversia en el seno de la ponencia

a principio sí que tenía la impresión de que podía ser un poco invasivo de la autonomía de la voluntad de las partes pero las fianzas que constituye una garantía para el arrendador también tiene que constituir una garantía para el arrendatario de que podrá recuperarla

por otra parte es preciso conocer

de vivienda que está en rotación que está en alquiler y que además eso genera una información que es crucial en el combate contra el fraude fiscal

controlar la evolución del parque de vivienda que se va alquilando y por otra parte tiene la facultad de proporcionar información muy valiosa

esta transacción hará que el voto particular decaiga y podamos

esta tesis luego mantenemos también nuestra enmienda número ochenta y tres de creación de un nuevo artículo sobre el registro de viviendas vacías esto fue una enmienda que presentamos a poco de registrar la iniciativa a la proposición de ley porque advertimos que efectivamente que toda la política de combatir el fenómeno de vivienda vacía

de vivienda vacía que permitiera llevar a cabo el control y seguimiento de estas de las que concurren los supuestos del cincuenta y seis de las viviendas permanentemente desocupadas

el texto refundido de haciendas locales plantea la posibilidad de establecer gravámenes

es decir que tampoco tampoco para el legislador estatal esto constituye un cuerpo extraño lo de aplicar una penalización a las viviendas que permanecen desocupadas por tiempo esto que plantea el texto refundido de haciendas locales

y en diferentes legislaciones se aplican modalidades muy distintas de penalización a esta situación porque como decía un fenómeno importante de viviendas vacías constituye un fenómeno cargado connotaciones negativas por lo tanto mantenemos la enmienda de creación de un artículo nuevo sobre el registro de vivienda vacía

claro entendíamos precisamente la necesidad de un régimen transitorio la aplicación progresiva

conscientes precisamente de que la aplicación del derecho subjetivo al igual que todas las medidas que van asociadas no podían aplicarse desde el primer día somos conscientes de la dificultad que va a tener en el tiempo

es de plantear un cambio en la cultura en la cultura dominante es decir y por lo tanto realmente yo convengo con usted señora llanos que es más fácil redactar una ley sobre el papel

poco a poco la cultura imperante en materia habitacional por eso mantenemos el voto particular a la disposición transitoria cuarta y bueno finalmente viene también nuestro voto

decir que esta que no aparece en el dictamen y que nosotros defendemos

de forma bastante exhaustiva lo que la ley pretende y además plantea su estructura y su sistemática

y es una necesidad básica a la que no todo el mundo accede que sobre esta cuestión se puede plantear mucho pero

lo importante más allá de las declaraciones de principios

a lo que es el texto articulado por lo tanto nosotros mantenemos el voto en particular a la exposición de motivos

puede llamar la atención el hecho de que en relación a la vivienda vacía esta exposición de motivos se refiere como que no es un hecho realmente significativo desde el punto de vista del derecho subjetivo pero es necesario ajustar oferta

el parque de vivienda vacía sabiendo sí que hay unos porcentajes mínimos de rotación para vivienda en alquiler y venta que son digamos en fin unos ratios técnicos

diríamos que sería vivienda vacía de carácter friccional mientras está

apela a la declaración de los derechos humanos y esta no debiera de ser tampoco una invocación meramente de estilo sino que si cree realmente

se verá que no es un detalle menor es decir que además de la constitución y todas estas cosas nosotros hemos inscrito grandes digamos pronunciamientos pero claro si como digamos

elemento simbólico la declaración de derechos humanos que plantea desde hace muchos años el derecho a la vivienda y ese derecho a la vivienda a la hora de garantizarlo hay que crear los instrumentos precisos la ley por supuesto como toda obra humana

y está lejos seguramente de resolver todos los problemas que en esta materia pueda haber pero sin duda representa o sea un esfuerzo claro una intención inequívoca de ir en la dirección en la que han planteado otras legislaciones que es que realmente esto por mucho que se quiera ridiculizar y llevar al absurdo lo que aquí surge o sea es perfectamente homologable

claro que las mayorías y las aritméticas son las que

pero ya lo dije en la comisión no hay mayorías aristocráticas unas sobre otras son mayorías y las mayorías que representan por lo tanto mayorías sociales mayorías ciudadanas valen tanto unas

porque si no vamos a llegar a la conclusión de que hay mayorías cualificadas según quien las componga y otras mayorías que resulta que son de baja cualificación porque las componen otros y nosotros en eso no estamos de acuerdo

han coincidido cuestiones programáticas ha habido un toma y daca efectivamente en las posiciones de los diferentes grupos usted mismo ha reconocido

al menos de este ponente ha pasado lo mismo con el grupo nacionalista

pero que también ha incorporado importantes enmiendas

y por lo tanto la idea general ha sido la de lograr un gran consenso pero ojo con una serie de elementos nucleares y el derecho subjetivo en el que usted insiste que no es necesario este precisamente es uno de los elementos sobre los que más discute la doctrina si no se configura un derecho subjetivo en la ley

claro clarísimo hay también otra aportación de los colegios profesionales de agentes de la propiedad inmobiliaria que requieren el apoyo de todos los grupos y que lo han recabado

estas son las cuestiones digamos nuevas nosotros mantenemos las enmiendas como digo y los votos particulares esperando que gocen del apoyo suficiente para darle sentido cohesión y coherencia al resto del dictamen que

adolecería digamos de una cierta incoherencia por lo tanto espero encontrar el apoyo a estas enmiendas y votos particulares que planteo nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna

se deben conocer las consecuencias jurídicas y económicas para las personas afectadas su incidencia sobre el punto de vista presupuestario y sobre la distribución de competencias entre las administraciones afectadas se viene diciendo para motivar la existencia de esta ley que no existe en euskadi una ley de vivienda pero ello no debía servir de justificación a nuestro modo de ver la justificación debieran ser

pues ese sería realmente el problema y sin embargo sobre ello nada se ha justificado en la proposición de ley a nuestro juicio

para nuestro grupo la vivienda es una parte sustancial de las políticas sociales

facilitar la existencia de viviendas suficientes para la sociedad vasca de los próximos años satisfacer la demanda de vivienda en alquiler o en propiedad prestando especial atención a las familias modestas aquellas cuyos ingresos son inferiores a treinta y nueve mil euros anuales

pero también debemos trabajar para satisfacer la necesidad de vivienda del resto de nuestra sociedad y en este sentido

porque para ello en primer lugar es preciso realizar un diagnóstico

y nada de esto se ha tratado en esta proposición ni los retos políticos que se nos plantean deben estar unidos

es el primer elemento de un espacio construido que lo coloca en el centro mismo de la vida urbana del urbanismo por su papel económico

y además de su importancia en la economía y el empleo se utiliza como patrimonio que se administra y produce unas rentas o ingresos

y el modo de trabajo el siguiente detectar los problemas y carencias en la materia identificar los niveles de responsabilidad político administrativas de lo acontecido hasta ahora

asignar obligaciones separadamente a cada administración evaluar los efectos de ello

pero dentro de una visión de conjunto a la proposición de ley de vivienda de euskadi le falta esa visión de conjunto le falta una visión estructural del sector de la vivienda así por ejemplo se dice que el sistema vigente no ha funcionado

en esencia se limita casi exclusivamente a cambiar el nombre a la protección pública

y a las nuevas se les va a llamar viviendas de protección social con el agravante

de igual modo se olvida de los agentes privados que interviene en el proceso de provisión de viviendas a la sociedad y recordemos que de cada cuatro viviendas que se han construido en euskadi en los últimos veinte años

no existe un compromiso de colaboración con iniciativa privada para conseguir la existencia de suficientes viviendas para todos según los datos proporcionados a todos los parlamentarios esta misma semana seguían inscritas en etxebide

en demanda de vivienda de las cuales doce mil cuatrocientos ochenta y siete

esta ley debiera servir para ofrecer a ese colectivo unas perspectivas

no se visualiza que estas perspectivas puedan cumplirse tampoco trata esta ley

asistencial se abstiene de abordar la problemática de las viviendas libres las relaciones entre particulares que tienen por objeto de la compraventa de las viviendas libres que supone nada más y nada menos que el setenta y cinco por ciento del total

y particularmente grave nos parece la defectuosa regulación del capítulo de competencias planificación y programación en materia de vivienda

en nuestra opinión esta proposición no reúne la calidad suficiente para merecer nuestro apoyo el texto propuesto no es que sea

técnicamente malo no aparece como un todo coherente sino como algo

osotasun koherente bat izatetik urrun produktu nahasgarri bat el texto que se somete a la aprobación incorpora sin más

demandas de colectivos ciudadanos y en muchos casos su texto es más propio de una proposición no de ley que de una ley propiamente dicha o como dice un amigo mío

mandatos políticos lisa y llanamente contraproducentes para ofrecer una solución real al problema de la vivienda en euskadi participa de algunas viejas obsesiones como la que todas las viviendas protegidas deben serlo en régimen de alquiler si todas las ayudas públicas se destinan al alquiler cómo y cuándo se va a atender a los doce mil quinientos demandantes de vpo en propiedad inscritos en etxebide

participantes en la ponencia para conseguir un compromiso a largo plazo la actuación del grupo socialista fundamentalmente se ha basado simple y llanamente en la imposición de su propuesta

permanentemente en el único voto de setenta y cinco que es el de upyd

va a provocar que se impidan las transformaciones de calado sobre la base del consenso político y social que son las que en realidad pueden servir para resolver la problemática de vivienda para una o más generaciones pretender transformar la compleja realidad del mundo de la vivienda mediante disposiciones que se publican en el boletín oficial del país vasco

ni de otros muchos colectivos puede quedar bien ante la parroquia de uno pero poco más creemos que en este caso se puede hablar de postureo legislativo porque en más que para cambiar las normas en materia de vivienda

en un momento determinado o para obtener una mayor popularidad política creemos que en esta ley no se emplea la técnica legislativa adecuada y se establece una gran inseguridad jurídica que producirá efectos negativos en el desarrollo de la actividad tanto de los públicos como de los privados inclusive señoría en ese texto hoy se va a aprobar una cosa y la contraria al mismo tiempo

pero vayamos al análisis de los aspectos más significativos de la proposición sobre el llamado derecho subjetivo y décimos llamado de derecho subjetivo porque la comisión jurídica asesora

lo primero que debe decirse al respecto para gran decepción de los que apoya esta proposición

es que en esta ley no se crea ex novo un derecho subjetivo a la vivienda

como la legislación social aplicable en euskadi por lo que se refiere a esta última el artículo treinta de la ley para la garantía de ingresos e inclusión social aprobado por este parlamento el veintiséis de diciembre de dos mil ocho siendo lehendakari juan josé ibarretxe constituye la prestación

que tiene por finalidad facilitar a las personas el acceso a la vivienda en alquiler

con esta proposición desde nuestro grupo creemos que las ayudas públicas deben dirigirse fundamentalmente a las personas y no tanto al hormigón puesto que nos parece más justo que las ayudas se amolden a la situación económica cambiante de las familias

y así se planteó como digo en el dos mil ocho por tanto no es cierto como aparece reflejado en muchos medios de comunicación

es más lo propicio en el año dos mil ocho como digo nos oponemos a la forma propuesta en ese texto para conseguir ese objetivo

que los beneficiarios cumplan determinados requisitos como son

hallarse empadronado o empadronada y tener tres años de residencia efectiva y una propuesta que vaya incardinada en el vigente sistema de ayudas sociales

se relacione con los índices utilizados para las restantes políticas sociales además

porque seamos serios se debe legislar con datos a la hora de aprobar una proposición de ley debemos disponer de la información necesaria para estimar lo acertado de la medida y entre otras cuestiones debemos conocer el impacto económico de la propuesta y qué impacto económico va a suponer en las arcas públicas

el coste mínimo de esta ley para el periodo dos mil quince dos mil veinticinco sería de setenta y cinco millónes de euros más

con la incorporación de las últimas enmiendas que son difíciles de calcular su impacto porque son

se estima en unos ochocientos sesenta y cuatro millónes y recordemos que el pasado año se han destinado a tal efecto unos noventa millónes por lo que sería necesario aumentar los presupuestos en la materia hasta los ciento cincuenta millónes de euros anuales y este es el impacto

va a suponer también importantes variaciones de gasto para los municipios y quizás también de sus ingresos la aplicación de esta ley en los términos propuestos y su relación con la ley de garantía e ingresos va a plantear un conflicto social

deberán dejar de percibir las ayudas que reciban para el pago del alquiler de las viviendas que ocupan

realizada en el documento es tan deficiente que a la entrada en vigor de la ley existirán dos derechos subjetivos uno el propio de esta ley y otro el de la ley de garantía de ingresos

sobre la expropiación temporal del uso de la vivienda en los procedimientos de desahucio

el uso de viviendas inmersas en un procedimiento de desahucio pero no solo en los casos de impago de las cuotas del prestamo hipotecario sino también

de la vivienda cuando un inquilino no puede pagar al casero el alquiler

de las discusiones técnicas sobre la fórmula de articularlo con estas perspectivas

en alquiler si existe el riesgo de que además de no cobrar el alquiler el gobierno lo puede expropiar la misma durante tres años en favor del inquilino moroso ustedes creen en serio que esta es una forma de fomentar el alquiler de viviendas vacías ante los casos de riesgo de exclusión social

nosotros tenemos una propuesta propia nuestras medidas van encaminadas a resolver los problemas de densidad de habitación de las personas

que han dejado de pagar sus cuotas como a los inquilinos que no pueden pagar al propietario y ello porque entendemos que el daño infringido a las personas desalojadas el daño

es similar en ambos casos las medidas propuestas son la mediación entre las partes en esencia

a los afectados las ayudas económicas y finalmente el ofrecimiento de una vivienda en alquiler del parque público nosotros priorizamos siempre las actuaciones preventivas

y de la asistencia a los necesitados de ayuda en esta materia por lo que se refiere a la problemática de vivienda vacía

según el último informe sobre vivienda vacía elaborado por el gobierno el año dos mil trece existen en la comunidad autónoma noventa y uno mil viviendas vacías de las cuales son gestionables susceptibles de movilización inmediata por parte de las administraciones para su potencial oferta en el mercado de vivienda

nosotros somos partidarios de promover estímulos e incentivos para que las viviendas vacías se incorporen al mercado a fin de satisfacer

mediante la creación y potenciación del programa bizigune en el ámbito tributario mediante medidas incentivadoras en varios impuestos como en el irpf

porque se define el canon del siguiente modo como una imposición a cargo de los ayuntamientos que gravará a las viviendas deshabitadas y los ingresos por este concepto contarán el patrimonio municipal de suelo se trata de una obligación que se impone a los particulares

es decir queda configurado como un impuesto municipal en toda regla

y llegado a este punto debemos que recordar que en euskadi la regulación del régimen tributario municipal corresponde a las instituciones forales y a los territorios históricos y esto no es una cuestión que se regule en la ley de territorios históricos

en definitiva que a nuestro juicio este parlamento está estableciendo un nuevo impuesto municipal una intromisión en las competencias de los territorios históricos y todo ello con independencia que en el territorio histórico de gipuzkoa los ayuntamientos pueden exigir y de hecho algunos ya lo exigen el recargo de la cuota líquida al ibi para las viviendas vacías es decir se produce un supuesto de doble imposición algo que está legalmente prohibido

consideramos que la política de rehabilitación va a ser fundamental en la futura estrategia de vivienda y por eso hemos propuesto

además con el fin de hacer más atractivas las actuaciones de rehabilitación para los

del quince por ciento al diez por ciento en suelo urbano consolidado

también hemos propuesto una serie de modificaciones para evitar incongruencias e inseguridad jurídica tanto para el aplicador de la norma como para los particulares ante las numerosas contradicciones entre el texto de la proposición y la regulación básica que dimana de la ley

del texto en relación con la citada ley hirur para aquellas viviendas

ello va a obligar a los ayuntamientos a prohibir la ocupación residencial de muchas viviendas llevando la inseguridad y la zozobra a muchos hogares que hoy no tienen esa preocupación sobre la relación de la vivienda de protección pública con el planeamiento urbanístico planteamos reducir los actuales porcentajes para vivienda de protección oficial del setenta y cinco al cincuenta y cinco por ciento en suelo urbanizable

previsto en la vigente ley del suelo así mismo proponemos otorgar mayor protagonismo a los municipios en la determinación de estos porcentajes con una doble finalidad

planteamos la reducción de los estándares mínimos de vivienda protegida en dos casos

cuando no exista demanda de vivienda protegida en el municipio porque no tiene mucho sentido señorías

demandantes de vivienda sociales e introducimos

con el interés general en la construcción de viviendas y la función social de la propiedad respecto a las enmiendas presentadas decir en primer lugar que mantenemos todas las enmiendas nuestras excepto las números quinientos cuarenta y siete y quinientos cincuenta y uno que las retiramos apoyaremos la disposición transitoria primera sobre el papel de las empresas inmobiliarias que es una enmienda

apoyaremos también el voto particular del grupo socialista sobre el depósito de fianzas así como

de aquellas que nos parecen más adecuadas para la consecución del objetivo de satisfacer

concretamente son las números ochenta y siete ciento dos ciento tres ciento cuatro ciento cinco

ciento treinta y cinco ciento treinta y seis ciento treinta y ocho ciento cuarenta y cinco ciento cuarenta y ocho ciento cincuenta y uno ciento sesenta ciento sesenta y uno ciento sesenta y dos

ciento ochenta y cinco ciento ochenta y ocho ciento noventa y seis doscientos uno

y votaremos en contra de todas las demás enmiendas

realizado por todos mis compañeros en la ponencia aun cuando el resultado

sinceramente con honestidad en la consecución de un buen texto aunque como digo no sea de nuestro agrado y pensamos que va a traer mucha dosis de inseguridad y va a traer muchos problemas para la resolución de los problemas que pretendíamos

los que hemos formado parte de esta ponencia que da lugar a este texto

efectivamente creo que así ha sido y creo que la voluntad de todos los grupos ha sido tratar de acordar el mejor texto posible que sirva para solucionar los problemas de la ciudadanía ese ha sido al menos nuestro empeño y ciertamente nos hemos comprometido en ello

no les gusta y han deslizado una serie de adjetivos que nosotros no compartimos se ha dicho que este es un texto técnicamente malo

que es papel mojado que es puro postureo y que incluso es demagogia por nuestra parte hay el menor interés de hacer ningún tipo de demagogia en relación a esta cuestión lo que tratamos es de resolver los problemas relacionados con la vivienda como consecuencia de los cuales durante los últimos años ha habido miles de ciudadanos que han sufrido demasiado y por lo tanto nuestra voluntad ha sido tratar de dar solución a esos problemas seguro que la ley es mejorable seguro que algunas de las enmiendas

no se han incluido podrían haberse incluido pero en todo caso creo que el texto que finalmente vamos a votar es coherente y en todo caso creo que vamos a tener una ley

y jurídicamente segura por mucho que algunos de los portavoces insistan en lo contrario creo que el texto es seguro jurídicamente avanzado

los problemas de la ciudadanía y que incorpora como decía antes tres asuntos que nosotros consideramos esenciales más allá de que haya otras cuestiones digamos que nosotros consideramos que no son tan importantes el hecho de que finalmente se haya incluido el derecho subjetivo

dejando al margen lo destinado a la rehabilitación o el hecho de que se hayan incorporado una serie de medidas políticas avanzadas para evitar desahucios en el futuro hace que

y hace que efectivamente votemos a favor de esta ley de vivienda quizás lo más sencillo hubiera sido mantenernos al margen lavarnos las manos

mucho menos progresista quizás hubiera sido lo más cómodo pero nosotros no hemos querido adoptar una postura cómoda sino que nos hemos querido

a este texto nos hemos querido sumar y hemos intentado hacer valer nuestro único voto para que esas cuestiones que nosotros consideramos relevantes finalmente sean incorporadas a la ley vamos a ver en relación al canon por vivienda deshabitada debemos decir que para su aplicación deben cumplirse una serie de requisitos que están perfectamente claros y que son perfectamente garantistas

salvo que concurra causa justificada se dice que se considerará que concurre causa justificada para la desocupación continuada en el caso de las viviendas de segunda residencia así como en los supuestos de traslado de domicilio por razones laborales de salud de dependencia o emergencia social que justifiquen la necesidad de desocupar temporalmente la vivienda o cuando su titular la mantiene en oferta de venta o alquiler a precios de mercado así como en otras situaciones

es un texto lo suficientemente garantista y por lo tanto esas llamadas al miedo

institucionales nos han parecido que han estado absolutamente fuera de lugar han tratado de trasladar miedo al conjunto de la sociedad cuando lo que tenían que haber hecho es trasladar porque esta es una buena ley que va a tener consecuencias positivas además el canon es una medida relativamente habitual en otros países de nuestro entorno gobiernos social demócratas liberales y neoliberales mantienen políticas de este tipo al objeto de movilidad el parque residencial infrautilizado

a edificar de manera desmedida así en inglaterra una vivienda se declara vacía a los seis meses y al dueño le pueden obligar a rehabilitarla venderla

en francia se castiga los pisos que estén desocupados durante dos años en áreas de más de doscientos mil habitantes con déficit de viviendas en bélgica

con tasas que varían de un lugar a otro se puede llegar también a la expropiación

hasta el doble si el piso no lo ocupa nadie en alemania

en los cuales los afectados pueden renunciar a algunos derechos y asumir el uso de los pisos

este hecho ya está recogido en otros países de nuestro entorno ya digo

y no pensamos en absoluto que vaya a convertirse en papel mojado creo que va a tener consecuencias y consecuencias positivas para el conjunto de la sociedad es curioso que haya quien niegue

meses el derecho subjetivo a las ayudas a la conciliación por ejemplo cuando creo que el tema de la vivienda es un asunto lo suficientemente relevante es también curioso que haya quien

se recoja en ella el derecho subjetivo a una vivienda digna y sin embargo por parte del otro grupo el partido nacionalista vasco diga que el derecho subjetivo ya existe en euskadi nos parece una contradicción

deberá ser concretado por el propio gobierno vasco vía reglamento y nosotros estaremos muy atentos para ver exactamente cómo lo hace se dice también que esta ley va a suponer el incremento

relativos a la vivienda y se habla de un posible impacto económico incluso inasumible para las arcas públicas nosotros no lo creemos nosotros pensamos que se dedica

como debe ser se dedica mucho dinero a la educación como debe ser se destina mucho dinero al gasto social como debe ser y también tiene que dedicarse mucho dinero

y en concreto algunos deberán cambiar el chip y darse cuenta que este es un derecho de los fundamentales que debe ser protegido por parte del gobierno y por lo tanto evidentemente eso supone la disponibilidad de recursos económicos en fin recorten ustedes por otro lado

el gasto superfluo luchen más y mejor contra el fraude fiscal reduzcan las partidas destinadas a asuntos que son claramente menos importantes que este

o reduzcan de manera contundente todo aquello relacionado con las empresas públicas entes fundaciones de todo tipo que siguen pululando por nuestra geografía otro objetivo que colocar a los partidarios de un partido político u otro es decir hay mucho gasto superfluo en euskadi como para decir que esta ley va a suponer

muchos recursos económicos esto por lo tanto es fundamental efectivamente

recursos económicos a garantizar el derecho a una vivienda digna en fin en relación a las enmiendas presentadas por el resto de los grupos o que se mantienen en relación a las enmiendas del grupo socialista votaríamos a favor de su enmienda número ochenta y tres al artículo cincuenta y siete

del voto particular que mantiene el artículo cincuenta y cuatro

de esa transaccional votaríamos a favor del voto particular del grupo socialista a la exposición de motivos que

fue suprimido como consecuencia del voto contrario de eh bildu nosotros apoyaríamos que efectivamente vuelva a aparecer esa exposición de motivos y votaríamos también a favor de la disposición transitoria cuarta en concreto del voto particular socialista a la exposición transitoria

votaremos en contra de todas las enmiendas que todavía siguen vivas y que son del grupo nacionalistas vascos debo decir en este punto que creo que las enmiendas quinientos setenta y quinientos setenta y uno que mantiene el grupo nacionalistas vascos si no me equivoco están ya incorporadas al texto legal en todo caso votaríamos en contra de todas las demás

retiramos todas excepto la trescientos sesenta y siete para la supresión de la disposición transitoria relativa al depósito de fianzas de arrendamiento retiraríamos por lo tanto todas excepto la trescientos sesenta y siete y votaríamos en contra de todas las enmiendas

eh bildu en relación a las enmiendas del grupo popular nosotros votaríamos a favor nos gustaría votar a favor de la ciento veintiocho donde se incorpora

creo que es una buena ley creo que hemos incorporado asuntos muy relevantes y creo que va a servir para solucionar los graves problemas que miles de ciudadanos vascos han padecido

gracias señora presidenta buenos días de nuevo no creo ni que agote el tiempo porque la verdad

la postura del grupo popular la hemos dejado clara en la primera intervención hombre yo no dudo señor maneiro que usted considera que esta es una buenísima ley claro teniendo en cuenta que tiene su apoyo y todo lo que el señor maneiro apoya solamente por contar con su apoyo pues ya

de toda duda pero bromas de estas aparte

dos cuestiones claras desde el principio porque a los grupos de izquierdas parece que

que el resto de los grupos que no militamos en la izquierda no tenemos y es que parece que solo la izquierda en este país

es la defensora de los derechos además

y además solamente se puede defender los derechos en el modo que los defiende la izquierda y diciendo lo que dice la izquierda

ya es que no se garantizan los derechos usted ha llegado a decir señor itxaso que desde el grupo popular creemos que los derechos son meras declaraciones no no pero lo que no vale tampoco

cosa que quería dejar clara yo creo que he intentado tanto durante todo el debate de esta proposición de ley como hoy aquí en esta tribuna ser absolutamente respetuosa

que no diga o que no ponga de manifiesto lo que me parece alguno de los contenidos de la ley eso no quiere decir

ni un ejercicio como usted ha dicho señor itxaso de ridiculización en absoluto mi intención no ha sido ridiculizar en absoluto a los proponentes de esta ley o a los que van a votar a favor pero eso no quita para que si

o los objetivos que se van a conseguir finalmente con esta ley nosotros tengamos una opinión como grupo político no lo ponga de manifiesto aquí usted señor itxaso hablaba del derecho subjetivo a la vivienda como si eso fuera una panacea como

ese derecho subjetivo que sea posible reclamarlo jurisdiccionalmente

aquellos que no reconozcamos eso estamos negando a los vascos el derecho que tienen a poder acceder a una vivienda digna adecuada y accesible que además no es que se lo reconozcamos aquí en esta cámara es que la constitución se lo reconoce pero es que hay muchos derechos

y eso qué quiere decir que si no son declarados como tal derechos subjetivos no se satisfacen

ha sido un fracaso la de los gobiernos nacionalistas y la de su gobierno también y usted ha dicho que había mucha demanda insatisfecha sobre necesidades de vivienda y por qué no la hizo el gobierno socialista efectiva por qué no hizo efectiva esa demanda por qué no hicieron efectivos esos derechos qué estaban esperando a que fuesen declarados derechos subjetivos

se trata de voluntad de voluntad y eso

porque desde el respeto y sin caer en el absurdo yo no he dicho que la ley sea papel mojado he dicho

se puede convertir en papel mojado y claro que estamos aquí para hacer política

pero hacer política no es generar lo que a nuestro juicio al suyo no evidentemente

que si no se cuenta con una cobertura detrás pueden ser frustradas pueden ser frustradas y hacer política también

generar instrumentos jurídicos que luego no puedan verse impugnados por razones competenciales

o de los territorios históricos hacer política también es hacer que los instrumentos normativos que salgan de aquí luego no puedan ser impugnados que sean jurídicamente seguros y yo

su visión eso está claro pero lo que también es cierto es que

normativo que va a salir aprobado existe una afección clara al derecho de la propiedad que al margen de que sea un derecho que constitucionalmente y según el artículo ciento cuarenta y nueve regularlo y limitarlo corresponde al estado al margen de eso es tan fácil como decir no se cree en el derecho a la propiedad tiene que desaparecer el derecho a la propiedad vale plantéese que en la constitución el derecho a la propiedad desaparezca

es una opción pero lo que no se puede hacer

obviar que varios de los preceptos de esta normativa chocan total y absolutamente

pues hay ideologías progresistas que ya como le ponemos el adjetivo progresista ya

todo lo salva pero esas ideologías les gusta más

intervenir penalizar y obligar y a este grupo le gusta más fomentar e impulsar

las correctas puedo estar de acuerdo puedo estar de acuerdo

como no han sido correctas pues no hagamos medidas de fomento no lo que hay que es analizar por qué

no han sido utilizadas y en su caso corregir los errores errores cometido como digo

nosotros no estamos en el gobierno

en este momento concreto que preocupar si existe disponibilidad presupuestaria o no pero por responsabilidad y porque los ciudadanos no pueden tener expectativas que luego se vean frustradas tenemos que preocuparnos de si existe disponibilidad presupuestaria o no se ha dicho que yo puedo estar de acuerdo señor maneiro con alguno de los gastos que usted ha querido reducir sí puedo estar de acuerdo pero es que va más allá de esas reducciones entonces la pregunta está claro se trata de hacer priorizados claro señor itxaso

usted vía enmiendas va a realizar esas prioridades entonces no ha dicho aquí cuáles son las partidas

para tener los fondos económicos suficientes para hacer efectiva esta ley cuáles o qué va a hacer pedir un mayor endeudamiento hombre yo comprendo que ustedes son muy dados

que se encargan de sacar de la quiebra y de tratar de salvar lo que ustedes han dejado porque es que existe la mala costumbre de que las deudas hay que pagarlas sino dígaselo usted a grecia pero bueno ustedes se van y ya pagará el de atrás

en la oposición pues ya pagarán otros pero es que por responsabilidad hay que pagar hay que pagar entonces díganlo claramente

o suben los impuestos o rebajan de determinadas partidas

cuál de las tres opciones son las que ustedes elijen porque el dinero

quiero terminar

la izquierda en este país ni los que van a aprobar hoy esa ley aquí son los únicos que tienen la prerrogativa de garantizar los derechos de los ciudadanos en absoluto en absoluto nosotros somos firmes defensores de que la vivienda

digna adecuada y accesible tiene que ser un derecho de todos los vascos y especialmente los poderes públicos de euskadi tienen que garantizarlos

y nosotros apoyaremos las partidas destinadas a ello pero sigo diciendo desde el respeto y sin caer en la abstracción que esta ley no va a suponer
la garantía de ese derecho nada más y muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

que me esté facilitando la labor de separar nítidamente lo que son dos grandes concepciones que en la historia del pensamiento político se han venido

planteamientos conservadores planteamientos progresistas no sé si esto le dice algo pero en la historia de las ideas políticas esto está perfectamente acuñado a través del tiempo

con el debate con las cuestiones que ha planteado quiero efectivamente agradecer al señor maneiro el apoyo que va a dar a la enmienda y a los votos particulares que ha planteado para darle coherencia y consistencia al texto también a la señora beitialarrangoitia

expresamente me dice que no necesariamente debo de agradecérselo tengo que reconocer abiertamente que su grupo político ha mantenido una altura política y una altura de miras digna de ser reconocida y por lo tanto lo vuelvo a expresar una vez más

debo decir que izquierdas o no izquierdas izquierdas y derechas yo aquí acudo en calidad de socialista

viene de lo social y lo que nosotros hemos tratado de auspiciar es una ley que tenga un carácter y un contenido social si lo hemos logrado o no el tiempo lo dirá ciertamente a una ley se le hace necesario un desarrollo reglamentario y será por tanto

la acote la defina y permita su aplicación más justa más social y más cercana al propósito y al espíritu que anima a esta ley usted me ha hecho una serie de preguntas en el último momento de su intervención no quiero dejar pasar la respuesta el dinero la financiación las fuentes de financiación para esa cuestión que me plantean

con eso creo que se sufragaría y se financiaría más que suficientemente este cálculo que se hace que podrá ser real o podrá ser aproximado indudablemente

pero nosotros entendemos que en la jerarquía de prioridades

la necesidad habitacional es fundamental

tiene adolece de muchas cuestiones posiblemente desde un punto de vista técnico no seré yo ofrecer ahora mismo resistencia a todas esas cosas ya serán después los operadores jurídicos

de plantear sus lagunas sus dificultades o quizás de glosar y de elogiar sus avances porque de lo que se trata cuando se plantea una ley es precisamente de avanzar de avanzar de progresar

existente a usted señora llanos como a nosotros

comúnmente como constitucionalistas y hablando de los derechos quiero decirle que existen concepciones diametralmente opuestas sobre lo que es constitucional en materia de derechos

una invención de este parlamentario que en el tiempo en el que gobierna su partido hay una involución clarísima en materia de derechos y libertades públicas no voy a hacer una enumeración pero es que la concepción de los derechos no es la misma

por no hablar de esa sentencia de la que usted habla del tribunal constitucional que por cierto tiene cuatro votos particulares muy bien razonados sobre la progresiva recentralización del estado en materia de vertebración y distribución competencial porque claro

que el sacrosanto derecho a la propiedad pero al final terminan

esto es una cuestión de la planificación económica del estado que claro según eso en fin lo absorbería todo y vaciaría de contenido directamente las competencias que tienen atribuidas las comunidades autónomas señaladamente la nuestra en fin

es de aurora boreal por lo tanto la concepción de los derechos señora llanos no es unívoca no es unívoca ni siquiera a partir de un mismo

y nosotros hemos interpretado que en materia de vivienda hacía falta una ley como usted lo ha dicho

después de haber vivido los episodios que se han vivido después de haber conocido cómo está sociedad

falla no funciona a la hora de atender cuestiones esenciales porque el derecho a la vivienda es básico porque a él le van aparejados otros muchos sin el cual serían de difícil aplicación

y además en fin con más clarividencia que la que yo pueda exponer aquí que la ley

tendrá déficit como toda obra humana será necesario entonces

articular otras mayorías para que la perfeccionen y la corrijan pero esperando siempre que sea este el espíritu que anime a las anteriores modificaciones que sea para proteger que sea para garantizar y si realmente hay políticas de viviendas adecuadas si efectivamente se dan por supuesto que nosotros tenemos nuestras luces y nuestras sombras y tenemos también en fin

hay muchas cuestiones que a la hora de un gobierno no se terminan de concretar concretamente esta que viene hoy aquí no se terminó de concretar en la legislatura anterior pero la perseverancia la constancia que es la madre de todas las virtudes ha permitido

en esta otra legislatura y que con una mayoría yo lamento mucho ciertamente no lo digo por ustedes que creo que su posición política ideológica es netamente visible y reconciliable pero me conduele mucho más la posición del partido nacionalista vasco

y pienso que realmente su apoyo a esta ley además

rango de mayor consenso de alguna manera también retrataría como el partido que creo que son

desdice bastante de lo que es su acerbo y su tradición yo les animo a que en última instancia apoyen la ley o por lo menos llegado el caso el gobierno lleve a cabo el desarrollo reglamentario con la mejor voluntad y con el espíritu más fiel

señor itxaso decir que nuestro grupo está en contra es lisa y llanamente

y al respecto decir que el cuarenta por ciento de las ayudas sociales de todo el estado en la materia se otorgan en euskadi

y al margen de la distinta ubicación en el texto constitucional

y de los veinte años perdidos por el partido socialista para materializar el mismo me parece que puede ser un

y que a tenor de los resultados en euskadi podríamos calificarlo de satisfactorio resulta que en euskadi la educación comparando la vivienda

pero he aquí que en la red pública se haya el cincuenta por ciento escasamente el otro cincuenta por ciento se halla en la red privada de los cuales por cierto la tercer parte

es decir un servicio público prestado por unas empresas privadas con importantes ayudas públicas pues bien según esa proposición de ley va a resultar que no se van a destinar recursos públicos para las viviendas sociales

por qué se les obliga a que tres de cada cuatro viviendas sean de protección pública qué opinión les merecería a ustedes que si el departamento de educación obligase a la ikastola olabide por ejemplo impartir clases si esta decisión decidiese cerrar por no ser rentables seguramente que coincidiríamos en la apreciación

puedan materializar su derecho a la vivienda también para aquellas que no pueden materializarlo como digo

es decir también para aquellas familias que no pueden acceder a una vivienda pública por superar el nivel de ingresos

la sociedad nos exige que los impuestos que pagan los ciudadanos

que actuemos con rigor y seriedad en la gestión de los recursos públicos también

por lo que se refiere a la problemática de los desahucios y la temporal nosotros ya hemos

y el texto que nos proponen ustedes es un ejercicio de legislación para la galería

los proponentes deben decir a asociaciones de antidesahucios que el gobierno vasco no puede aplicar la medida propuesta

de la aplicación de esta futura ley sobre la normativa procesal civil y la hipotecaria a nuestro juicio el derecho subjetivo o el derecho de uso a la vivienda en la forma que aquí se reconoce no puede oponerse en un proceso de ejecución hipotecaria

a la posesión de la vivienda se debe oponer a una decisión judicial firme lo cual

y esto se regula en una legislación civil que es indisponible para la comunidad autónoma y estamos de acuerdo en que no tiene mucho sentido echar a la calle a la gente para que la vivienda quede vacía cierto es que proponer esta solución al problema

entendemos que es un asunto que a pesar de su escasa incidencia en euskadi

aunque esté mal decir que con las medidas que ustedes proponen no se resuelve el problema

decirle que en euskadi es escasamente el ocho por ciento del parque de viviendas que tiene el índice más bajo la media española es del trece por ciento la navarra

respecto del territorio resulta que tiene una mayor incidencia la vivienda vacía en los municipios

en los municipios de cuatro mil a diez mil es del cuatro y en las capitales en gasteiz el cinco por ciento en donostia el tres coma tres

es decir hay menos vivienda vacía allí donde la demanda es mayor por tanto

gestionables no resuelven el problema de la demanda por tanto es necesario construir más viviendas

y además el informe a nuestro juicio se queda alicorto digamos porque no analiza

teniendo en cuenta otros aspectos que tiene mucha influencia como son la calidad de las mismas si son habitables o no si cuentan con estándares de calidad aceptables

aunque ya se apunta en este informe como digo que aproximadamente más del cuarenta por ciento no dispone de gas por tubería o

que insistimos se ha pasado por encima y no se da una respuesta seria a este problema y

supone como decía en mi primera intervención un mandato político lisa y llanamente contraproducente para ofrecer una solución al problema de la vivienda en euskadi

tres de cada cuatro viviendas nuevas tengan el carácter de vivienda social

del derecho a la educación y además en régimen de alquiler alguien se cree que va a haber propietarios particulares dispuestos a construir esas viviendas en régimen de alquiler a los precios que se aplican

de empleo y la ley que se nos propone señorías va a superar

esta señora apoya destinar recursos públicos a la construcción de viviendas sociales por los particulares y ustedes no
y al hilo de esta cuestión me gustaría traer aquí una frase del señor burón viceconsejero de vivienda isiltasuna mesedez de la época del señor madrazo recogida en un trabajo suyo recientemente publicado y que dice lo siguiente

de la sociedad española ya sabemos a través de los estudios comparados de políticas públicas de vivienda que no puede ser la base de unas políticas públicas de amplio espectro sostenidas en el tiempo sin disfuncionalidades nosotros décimos lo siguiente si todas las ayudas públicas se destinan al alquiler cómo se va a atender

ustedes tienen un problema que es el que se niegan a aceptar la realidad

se están realizando en un mercado que opera al margen de lo que ustedes nos proponen y la realidad es que la gente demanda viviendas en propiedad no solamente los dos mil quinientos inscritos en etxebide

si la realidad no va acorde con la idea allá la realidad con su problema y parafraseándole podíamos decir si la ley de vivienda no se adecua a la realidad

al explicar la diferencia que existe entre las propuestas y las acciones cuando tienes responsabilidades de gobierno decía el problema es la realidad y tenía toda la razón

y otra muy distinta la capacidad de actuación nosotros intentamos dar solución a los problemas reales

los populistas son los que ofrecen soluciones falsas a los problemas reales y algo de esto es lo que hay en este asunto

sí señora presidenta retiro la ciento setenta y siete ciento setenta y ocho ciento setenta y nueve porque se ven reflejadas en la enmienda de transacción presentada bale oso ondo

bloques el primero sería el siguiente el compuesto por las enmiendas números ochenta y siete ciento dos

ciento veinticuatro ciento treinta y dos ciento treinta y tres ciento treinta y cinco ciento treinta y seis ciento treinta y ocho ciento cuarenta y cinco ciento cuarenta y ocho ciento cincuenta y ocho ciento sesenta ciento sesenta y uno ciento sesenta y dos ciento sesenta y tres

ciento setenta y uno ciento ochenta y cinco ciento ochenta y ocho ciento noventa y seis doscientos uno doscientos cinco doscientos treinta y seis y doscientos cuarenta y tres oso ondo por otro lado el resto de enmiendas

la ciento veintiocho por favor aparte orduan

hace dos años presentamos una iniciativa parlamentaria para instar al gobierno vasco a presentar en este parlamento un proyecto de ley de transparencia